egun on berriro las políticas de empleo que se estaban desarrollando en ese momento eran evidentemente de carácter continuista tenían que ver con los planes de empleo local tenían que ver

con los centros especiales de empleo no obstante sí es cierto que no aparece respondiendo a lo que se establece en su pregunta acuerdo de consejo de gobierno alguno previo al diecinueve de febrero del dos mil trece ya que la convocatoria de

y servicios de orientación para el empleo es lo que usted pregunta fue aprobada en el consejo de gobierno o mejor dicho el gasto superior a cinco millónes que permitía la orden fue aprobada en el consejo del gobierno de fecha de diecinueve de marzo de dos mil trece

en el boletín oficial del país vasco el miércoles veintisiete de marzo de dos mil trece eskerrik asko aburto jauna

sí la cuestión señor consejero es que el diecinueve de marzo

cómo se van a plantear una autorización de

y el resto un millón trescientos ochenta mil a crédito de compromiso para el dos mil catorce

no es muy coincidente con el hecho de que nos digan en esta respuesta que no permite tener crédito comprometido para años futuros en esta partida al haber sido suprimida por lo tanto yo ya sé que estoy haciendo más de una pregunta y que el reglamento solo permite hacer una que ya ha sido contestada pero

y que se dice que ha sido prorrogada por lo tanto comprenda nuestra perplejidad porque es difícil saber

si realmente esto es así es decir y si no hay créditos de compromiso porque no lo permite la ley de presupuestos cómo es que en el dossier de prensa del consejo de gobierno del diecinueve de marzo se dice

la convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo se aprueba como decíamos
se aprueba en primer lugar en el consejo de administración de lanbide

e inicia su tramitación a través del órgano de control económico el cierre presupuestario complicado

provoca que la aceptación por parte del órgano de control económico del expediente se atrasehasta mediados de marzo cuando nuestra intención era ponerla en marcha lo antes posible

sin hacer orientación laboral es cierto que en respuesta escrita a las preguntas formuladas por el partido socialista

ya están siendo aplicados en políticas de empleo pero también lo es que se respondiera así mismo en el contexto de las preguntas cinco y seis que para ello

para contar a la mayor brevedad posible con una convocatoria de ayudas similar a la última que se ha ejecutado la última ejecutada no era del dos mil doce

por lo tanto en materia de orientación laboral se está ejecutando en estos momentos dicha convocatoria anteriormente se intentó una convocatoria

por diversos motivos no continuar con la misma y lo que hemos hecho es proceder a

con la correspondiente orden regulando la misma se está ejecutando dicha convocatoria omo usted ha referido

de los cuales efectivamente a partir de ahora sí hay un proyecto compromiso para los años dos mil trece y dos mil catorce

que corresponden al crédito del dos mil trece y un millón trescientos ochenta mil ciento cincuenta euros

para dos mil catorce espero que esto en cierta medida sirva para aclarar algo ese pequeño

cinco seis y siete de la documentación remitida en su momento al partido socialista muchas gracias eskerrik asko aburto jauna

señora consejera de seguridad el pasado día veinticinco de marzo durante su comparecencia para explicar el proyecto de presupuestos anunció que no está recogida ningún tipo de partida destinada al borrado y retirada de pintadas pancartas y otros símbolos

no es nuestra intención prorrogarlos ni sacar este tipo de contratos y añadió la eliminación de las pintadas corresponde a cada uno de los ayuntamientos lo cierto es que esta decisión

para actuaciones propias como de la subvención a los municipios

al borrado de esta simbología señora consejera

al borrado y retirada de pintadas pancartas y otros símbolos de apoyo y de otros símbolos amenazantes y que amenazan y están amenazando estos últimos días a los demócratas y en concreto a los representantes democráticos de diferentes ayuntamientos señora consejera de verdad piensa usted que los ayuntamientos gobernados por bildu van a eliminar las pancartas y las pintadas pro etarras

fomenta y permite de verdad cree usted esto de verdad piensa usted que quienes realizan las pintadas amenazantes van a borrarlas es usted tan ingenua como para pensar esto son infinidad de pancartas infinidad de pintadas amenazantes infinidad de pintadas que defienden que en los últimos tiempos se están incrementando en las calles de diferentes

pintadas como esta señora consejera llevan varios días en nuestras calles partido popular partido socialista asesinos esto no se puede permitir señora consejera la ertzaintza tiene que hacer algo

usted es la máxima representante de la seguridad en el país vasco a día de hoy hay distintas calles y pueblos del país vasco que se han convertido

esto no puede ser considerado como un asunto municipal es usted la máxima responsable y por lo tanto le pedimos que evite esta vulneración de los derechos y este ataque

de la sociedad democrática gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak

bien señor maneiro mire no es una cuestión de fe

la retirada de carteles pintadas pancartas y otro tipo de símbolos es una competencia exclusivamente municipal

borrado supresión de esas pintadas es una cuestión de responsabilidad como le digo y es una cuestión

y a la coyuntura económica en que vivimos en esta situación

no podemos mantener la línea de ayudas de subvenciones a los ayuntamientos para la retirada de estas pintadas por tanto insisto siendo una competencia municipal es ahí donde reside la responsabilidad de la retirada de estas

gracias señora consejera me parece una absoluta vergüenza que usted se lave las manos en un asunto tan básico como este pintadas y pancartas amenazantes

y que siguen sin ser retiradas porque los ayuntamientos gobernados por bildu se niegan permanentemente insisto usted no puede lavarse

esto no es un tema municipal no es una cuestión de competencias señora consejera

de la seguridad partido popular partido socialista asesinos una absoluta vergüenza y por lo tanto le exijo que tome cartas

que se planteen estas pintadas que se realicen y que se mantengan en el tiempo como viene ocurriendo señora consejera amenazar a los demócratas

es amenazar a los demócratas usted es la máxima representante de la seguridad y por lo tanto le exijo que no se lave las manos

que esta vergüenza se mantenga en el tiempo y en las calles del país vasco

eskerrik asko señor maneiro no se trata de una lavada de manos ni muchísimo menos no dude

está cumpliendo con su responsabilidad

y sigue haciendo las labores de prevención en este tema también

de acuerdo a las instrucciones existentes previamente es decir una vez que se detectan este tipo de pintadas de pancartas que puedan suponer un enaltecimiento del terrorismo que menosprecien a las víctimas que resulten

habitual y establecido es informar requerir y notificar a los ayuntamientos para que procedan a su retirada

de dar cuenta a la fiscalía cuando esto no sucede la ertzaintza y el departamento de seguridad cuando esto no sucede

es el propio departamento el que procede a la supresión de esas pintadas así se va a seguir actuando por tanto le recuerdo

la labor que le compete en este término requerir a los ayuntamientos la limpieza la supresión de esas pintadas y en caso de que así no se produzca

presidenta señora consejera yo no sé si esta pregunta puede ser considerada una pregunta menor quizás mediaticamente

nos lo aclare lo cierto es que el proyecto de presupuestos presentado ante la cámara por el gobierno vasco prevé para este año un ingreso por multas y sanciones de tráfico

de euros cuando en el presupuesto del año pasado se incluyeron

diecinueve millónes de euros lo cierto es que durante la presentación del proyecto de presupuestos

llamó la atención de diferentes grupos que ciertamente se quedaron sorprendidos por este hecho y usted justificó ese aumento porque lo realmente ingresado en dos mil doce fue

no parece realista incrementar otros ocho coma dos millónes de euros

lo presupuestado como ingresos que provengan de multas y sanciones estamos hablando en definitiva de un incremento que parece que no está en absoluto justificado de más del cuarenta por ciento en concreto del cuarenta y dos por ciento en relación

en el ejercicio dos mil doce lo cierto es que durante la comparecencia hubo algún otro grupo que también le preguntó sobre la materia y en fin usted yo creo que no fue capaz de explicar

este incremento en la previsión de ingresos por multas y sanciones por lo tanto yo le insisto en este caso en el pleno de control para que explique cuáles son las razones que justifican tamaño incremento presupuestario en el asunto relacionado con la previsión de ingresos por multas y sanciones

explicarlo o usted no fue capaz de entenderme habría que aclarar la situación

hay dos partidas efectivamente multas y sanciones de tráfico y otra multas y sanciones de tráfico de radar fijo que en su conjunto efectivamente

una previsión que como le expliqué incluye las cantidades que se cobran en periodo voluntario

vía apremio por tanto hablamos

de euros es cierto y así se lo expliqué que en el presupuesto dos mil doce

los ingresos previstos y que se pensaban obtener en período voluntario de pago no así los que iban por vía de apremio y ahí diferencia en realidad por tanto si nos atenemos a los ingresos contabilizados en dos mil doce bien ha dicho son aproximadamente veintisiete millónes de euros por tanto

el presupuesto está ajustado totalmente a una situación real a una previsible situación real en cuanto lo que puede suponer

la recaudación por este medio y en ningún caso se está hablando de incrementar las sanciones sino de
atenernos a cuál es la recaudación en principio previsiblemente efectiva eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea

sí señora consejera se produce un incremento o no se produce un incremento del cuarenta y dos por ciento respecto a lo presupuestado en el ejercicio dos mil doce
cuál es el incremento entonces que se produce nos lo puede usted aclarar usted decía que hemos estimado ese ingreso no porque estimemos que vaya a haber más denuncias o más sanciones esto lo entendemos perfectamente

y una gestión más efectiva es decir que ustedes van a gestionar mejor de tal forma que se van a incrementar los ingresos previstos en más de ocho millónes de euros tan mal gestionó el gobierno anterior

usted se explicó mal sigue sin explicarse bien yo creo que no es que se explique bien o mal sino que no tiene argumentos para justificar

de multas y sanciones lo cierto es que ustedes vienen reiterando en los últimos tiempos que lo presupuestado por ingresos previstos debe ser riguroso

este caso concreto pensamos que este incremento de ingresos previstos que se plantea es voluntarista nada riguroso

y sanciones de tráfico y hoy lo cierto es que tampoco ha sido capaz

ese incremento del cuarenta y dos por ciento en relación a los ingresos previstos por multas y sanciones de tráfico a nosotros nos parece que es impensable que se produzca tal incremento

las personas viajan menos y desde luego van a tener mucho más cuidado que antes en relación a que se les pongan multas de tráfico por lo tanto me parece una previsión poco rigurosa

eskerrik asko porcentaje de incremento le he dicho que el año pasado el ejercicio dos mil doce contabilizados los ingresos aproximadamente veintisiete millónes de euros recaudados en multas

presupuestado para dos mil trece aproximadamente veintiséis millónes de euros más otra partida de un millón

y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros es decir veintisiete millónes recaudados en dos mil doce

para dos mil trece dónde está ese incremento del cuarenta y dos por ciento dígame usted si yo no

no contabilizan bien por tanto ya le he explicado cuál es el origen de esta diferencia y de por qué en el presupuesto dos mil doce esa cantidad

porque en el departamento de seguridad así se lo expliqué en la comparecencia en la explicación de presupuestos

no aparecía contabilizado el ingreso que se producía por la recaudación

ahí estaba la diferencia si usted compara esos dos presupuestos pero si nos atenemos a la recaudación real en el departamento de seguridad en dos mil doce

alude por tanto negando la mayor y partiendo de un análisis erróneo lógicamente yo no puedo darle otra explicación que esta

encantada de saludarle de nuevo bien desde el punto de vista formal yo voy a intervenir hoy en nombre del partido socialita del grupo socialista

le interpelo sobre todo en nombre de muchísimas personas esas personas que según sus palabras habrán de ser el eje central el eje único de su acción de gobierno personas consejero que son ciudadanas y ciudadanos de eibar de elgoibar de plaentxi de mendaro de bergara de azkoitia de azpeitia de deba de mutriku de elgeta de ermua de mallabia de zaldibar de berriz

de iurreta de durango de izurtza de mañaria de abadiño

de todos y cada uno de esos veinticinco municipios a los que supuestamente y espero que sea así el hospital de eibar habrá de dar servicio más de ciento noventa y cinco mil personas más

mayores perdón de sesenta y cinco años como yo creo que usted ya sabrá sola desde eibar consejero avalan esta interpelación también un número que supera ampliamente las ocho mil firmas que se han recogido pocos días y por iniciativa de una plataforma ciudadana como usted bien conoce de apoyo al hospital que en su momento ya

inmediato de la construcción de esta infraestructura sanitaria

uniendo más hasta alcanzar la cifra a día de hoy de veintiuno

que apoyan yo los voy a nombrar porque me parece que es de rigor

los hogares de jubilados beheko tokia el hogar de jubilado de ipurua unzaga la coordinadora de jubilados y pensionistas biztu asociación de jubilados voluntarios nagusilan consejo comarcal de mayores de debabarrena asociación de enfermos de fibromialgia de debabarrena asociación de ayuda afectados de parkinson de debabarrena

asociación eibar centro comercial abierto asociación de baserritarras eibarreses andirao

sociedad deportiva eibar asociación de antiguos alumnos de la escuela de armeria

además y como usted también sabe el ayuntamiento de eibar decidió el pasado catorce de marzo a través de su junta de portavoces

pnv y pp salvo bildu que votó en contra en fin sin comentarios consejero como le decía hoy intento traer humildemente a este parlamento una preocupación que viene

y a la que el anterior gobierno intentó dar una solución planificada

esto es un déficit estructural en todo euskadi pero concretamente

que conforma el área de influencia del hospital como le digo que son las comarcas del alto deba

artibai yo con el debido respeto he de decirle que si su objetivo

quiero empezar bien con usted y quiero empatizar y además como sé que a usted le gusta compartir yo también quiero compartir con usted y por tanto sabiendo que no le gusta hablar de subagudos vamos hablar de crónicos que es una palabra que le gusta más vamos hablar concretamente de este hospital de crónicos yo creo que no cabe duda y que usted y yo podemos compartir sin duda que existe una necesidad de centros hospitalarios

complejas son enfermos pluripatológicos y esto se deriva fundamentalmente y afortunadamente de un aumento de la supervivencia que obviamente

obligatoriamente los poderes públicos estamos obligados a dotar de una

es donde se enmarca esa estrategia de crónicos que el gobierno socialista inició y que actualmente convendrá conmigo consejero es la madre del cordero de toda sanidad pública que se

pacientes pluripatológicos una atención especializada e integrada en un circuito que está perfectamente planificado

y con expertos en recuperación funcional que obviamente lo que se consigue es mejorar la calidad de vida

y de centros hospitalarios como este hospital que están pensados no solamente para curar sino también

es necesario que se ponga este tipo de hospitales en marcha que están

además pacientes que son expertos en su propio autocuidado y además cuidan a los cuidadores en eso estamos yo creo que todos de acuerdo

además de que se aumenta la capacidad y movilidad del paciente

hospitales contribuyen además a evitar ingresos y reingresos en gran cantidad de número y a mejorar la calidad de vida estas personas que padecen estas enfermedades crónicas yo creo que no hay duda

en el caso del hospital de eibar se permitiría extraer pacientes crónicos

que carece de dotaciones de camas suficientes y además hay momentos puntuales de picos muy importantes que ocurren casi todos los años

tenemos claro que esto es una vocación diferente de hospital una vocación diferente para una

y un equipamiento sanitario diferente si tenemos claro que la vía de una estrategia

vamos a discutir usted y yo nunca por tanto yo lo que no termino de entender es que si a fecha dos mil diez

para constatar la oportunidad de construcción del hospital eran rotundos abía una previsión de ochenta y dos camas más de tres mil ciento cincuenta consultas externas veinte

sesiones de rehabilitación ambulatoria por ejemplo qué es lo que ha pasado hoy

vamos a seguir poniendo parches vamos a seguir diseminando pacientes por todo el territorio de euskadi vamos a seguir prestando una atención dispersa una atención disgregada eso no es plan y además lo peor de todo consejero es que yo lo que quiero es que usted no tiene un plan no tiene decidido qué es lo que va a hacer

ya hemos dejado claro que era necesario orque por lo menos eso era lo que se establecía en un informe bastante exhaustivo es decir había un plan funcional etcétera

y el ayuntamiento de eibar suscriben un convenio para la construcción de este hospital que supuestamente es absolutamente

de eibar se compromete a adquirir un solar adecuado

con todas las cosas que eso conlleva como por ejemplo una modificación del plan general

el ayuntamiento de eibar ha cumplido escrupulosamente con todos y cada uno de los compromisos

ha incumplido con el principal que es la construcción del hospital y lo ha incumplido no sabemos por qué razón ni por qué no lo ha incumplido

ni motivo ni razón había solar la obra está adjudicada

y eso significa que hay dinero consejero hay dinero tiene concedida la licencia de obras que por cierto está en prorroga porque también se ha solicitado luego todo está preparado para que esa infraestructura

una infraestructura que va a mejorar sustancialmente la vida

también luego lo único que falla aquí teniendo todo esto

teniendo solar teniendo

es voluntad política lo demás son excusas por eso

de las que usted quiere acordarse y yo también que

es por lo que le pregunto cuáles son las intenciones consejero
en cuanto a la construcción del hospital de eibar gracias eskerrik asko

egun on berriro ere antes de avanzar en mi respuesta

permítame que transmita públicamente mi total respeto a la población de debabarrena y a la población de eibar

bizilagunei a lo largo de los próximos minutos voy a intentar responderle nuevamente a la construcción del hospital de eibar al parecer no debió quedar clara cuál era la decisión al respecto que el departamento de salud del gobierno vasco transmitió en la presentación de presupuestos y en la en la comisión de salud y consumo al respecto por lo que

es que el departamento de salud en tanto en cuanto no tenga aprobado o prorrogado su presupuesto ya transmitió que no tenía tomada ninguna decisión firme definitiva ni sobre el hospital de eibar ni sobre ninguna otra

nunca hemos dicho que no vamos a ejecutar bajo ningún concepto el hospital de crónicos de eibar tan solo hemos dicho y creo que con una cierta claridad que esta infraestructura no está contemplado este año en el presupuesto que hemos presentado porque no tiene la financiación previstas señora gallastegui usted me lo dice a mí nos lo repetimos los dos pero no es verdad

y en los presupuestos del gobierno no hay financiación prevista para el hospital

eraikiko además tal y como ya anuncié en la comisión de salud y consumo nos parece fundamental antes de tomar cualquier decisión definitiva

y yo conozco el informe que se hizo previamente pero usted y yo conocemos la secuencia en la anterior legislatura

vamos a hacer un hospital en eibar dos años después se presentó el informe y posteriormente a escasas semanas de finalizar la legislatura

pero lo planteé vamos a realizar un informe exhaustivo

creame y lo voy a volver a repetir señora gallastegui que no cuenta este año

no en este ejercicio presupuestario en lo que hemos dicho por activa y por pasiva que vamos a priorizar aquellas infraestructuras que ya están empezadas por cierto puestas en marcha la legislatura anterior por el partido socialista y además

las que están en el presupuesto empezadas que empezaron ustedes las compartimos y creemos en su idoneidad pero el resto de momento deben esperar

podemos hablar de un hospital con camas en cada uno de los pueblos de euskadi la respuesta es no tenemos que poner las que estimemos necesarias para las necesidades de las personas si en cualquier pueblo en la asociación de jubilados preguntamos si quieren un hospital de crónicos usted y yo coincidiremos

va a ser sí además en el departamento de salud mientras estemos nosotros vamos a ser responsables y lo hemos dicho no vamos a gastar lo que no tenemos ni vamos a levantar infraestructuras que dejen vacías otras existentes

antes de levantar cualquier infraestructura con un coste tenemos que tener claro que ese servicio no se está prestando en tiempo forma ubicación y accesibilidad en las condiciones adecuadas para las personas esas en las que usted y yo pensamos y nos debemos bien llegados a este punto

que existe la demanda poblacional necesaria lo expuse en la comisión parlamentaria el pasado

pero voy a repetirlo el proyecto del hospital de crónicos de eibar surgió con la vocación de prestar asistencia sanitaria a los pacientes crónicos de debabarrena

como también ha explicado la población global de estos municipios se estimó en ese informe

y en el mismo informe figura que treinta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro sería mayores de sesenta y cuatro años de acuerdo al proyecto planteado

entre setenta y dos y noventa camas el hospital de crónicos se presentaba como un concepto asistencial novedoso aunque realmente

el nueve de julio del dos mil diez titulado atención al paciente subagudo en el país vasco en dicho informe se incluyen una serie de paciente bajo el denominador común de paciente subagudo algunos de estos son pacientes difíciles de deslindar respecto de los que ya se están atendiendo por ejemplo en la osi de bajo deba

en el hospital de mendaro también entendemos que para valorar la necesidad hay que tener en cuenta los centros residenciales existentes en debabarrena como usted seguramente conoce

y cuatro centros de día en conjunto con una capacidad para quinientos veintinueve pacientes y que a tenor de los datos del dos mil doce

o dicho de otra manera hay cuarenta y uno camas libres todo el año

la pasada legislatura el anterior departamento de sanidad puso en funcionamiento unidades de media estancia

no este consejero el anterior departamento puso

de alto deba y bidasoa unidades de media estancia que lógicamente

por tanto la primera reflexión nos debe llevar a intentar evitar

antes de tomar la decisión en tercer lugar habría que considerar también otros dispositivos existentes en gipuzkoa de un escalón existencial superior para los cuidados sociosanitarios

pretendo dispersar los pacientes por toda la provincia pretendo hacer un informe que refleje lo que necesitamos para que sus señorías se hagan una idea de las necesidades de recursos para pacientes crónicos en debabarrena en el año dos mil doce

hemos contabilizado once pacientes en todo el año que han generado ochocientos ochenta y seis estancias

son también atendidos en la fundación matia y en las camas de media estancia de amara en el hospital donostia

y alto deba estos dos últimos centros han destinado para este uso entre seis

en definitiva pese a lo previsto en el informe del paciente agudo en el país vasco antes mencionado consideramos que no todos los tipos de pacientes susceptibles de media estancia tienen el mismo tipo de necesidad porque ese informe contemplaba como dijimos en la comisión de salud y consumo los pacientes

no debemos mezclarlos con el resto de pacientes por todo lo expuesto estimamos que serían necesarias

lo que daría unas necesidades de alrededor de diecinueve camas así

serían entre las nueve camas que se han utilizado en el dos mil doce utilizadas no es un invento mío

nueve camas en el resto de recursos de media estancia o sociosanitarios de alta complejidad de gipuzkoa y las diecinueve camas que nosotros hemos estimado pero bueno

y me vuelvo a reiterar hasta no contar con un análisis más exhaustivo no vamos a tomar una decisión definitiva sin menoscabo de que este año no vamos a poner en marcha esta infraestructura aurten printzipioz ez eskerrik asko

le agradezco sus respuestas pero tengo que decirle consejero que lamento muchísimo tener que decirle esto

dialéctica política usted ha venido aquí con los mismos argumentos con los que fue a la comisión de sanidad

que lo único que vienen a decir es que ustedes están derivando pacientes crónicos a hospitales de agudos y a residencias de ancianos si eso es lo que están haciendo le estoy diciendo lo mismo que le dije en aquella ocasión

en compartir cuál era el criterio de asistencia de los enfermos crónicos y

no es un criterio residencial ni es un criterio de hospital de agudo esta clarísima yo creo que la comunidad sanitaria lo tiene absolutamente claro si no compartimos el punto de partida

andamos fatal porque claro usted me está diciendo que

tienen enfermos con patologías crónicas

en un hospital de agudos o si no en un centro residencial eso no

que por cierto la estrategia siete era donde se establecía cómo tenían que ser

estos enfermos luego si no partimos de ahí yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes

usted no está hablando de la estrategia de crónicos está hablando de otra cosa es decir está hablando de atender a pacientes como si fueran

dependientes o si no enfermos con un pico de enfermedad puntual estamos hablando de pacientes que necesitan tratamientos interdisciplinares multidisciplinares que están

es que es una filosofía absolutamente distinta

ahora con los cálculos que hacen obviamente claro es que si ustedes mandan

o diez o ninguna eso depende eso depende en cualquier caso

no sé cómo decírselo vamos a ver si en el año dos mil diez teníamos el problema que teníamos usted hablaba primero además

de subagudos o de crónicos en cada pueblo de euskadi no oiga no estamos hablando de un espacio que

es el núcleo central de área de influencia de veinticinco municipios que no es moco de pavo

luego vamos a ser serios no se trata de poner un hospital ningún sitio yo no tendría ningún problema que fuera en otro sitio prefiero que esté en eibar porque además yo vivo allí es algo razonable pero es que me parece que además es el mejor sitio para ubicarlo pero si lo ponen en durango no tendría ningún problema tampoco

es decir de lo que se trata es de acercar lo máximo y que todo el mundo los ciudadanos de euskadi tengan bien el acceso a unos determinados servicios en condiciones de igualdad hablaba usted

antes las teníamos o es que el informe exhaustivo que se presentó con un plan funcional y que determinaba la existencia de esas necesidades no vale usted está diciendo que no tiene los datos usted habla de

cuáles son los datos que le dan a usted los parámetros para establecer prioridades cuáles son los datos que le dicen a usted que esto no es necesario habla usted para afear un poquito

que esto era una apuesta electoral y que por lo tanto

el carro antes de los bueyes me ha parecido entender

las apuestas electorales no se hacen para ganar elecciones se hacen

lo que los partidos o los grupos que se presentan o las

coaliciones plantean porque consideran que es lo mejor para los ciudadanos y si hablamos solamente de réditos electorales

en el foro de la política por lo tanto ese comentario yo
creo que está fuera de lugar gracias eskerrik asko gallastegui andrea denbora amaitu zaizu erantzuteko

y de verdad que no estoy en contra de

simplemente intento en este caso aplicar un criterio riguroso en un momento económicamente muy complejo y probablemente si se hubiera iniciado estaría hablando de otra cosa pero no tiene presupuesto no está iniciado con los presupuestos que hemos presentado debe esperar

con el debido respeto debo decirle yo no tengo los pacientes dispersos por la provincia de gipuzkoa porque yo llevo ciento siete días en el gobierno yo los tengo donde los tenía el anterior gobierno es así y me parece bien además seguramente yo no hubiera hecho otra cosa pero no me diga que usted los tiene dispersos porque yo los tengo donde estaban yo los tengo donde estaban es más yo le he dado los datos del año dos mil doce

luego si en el dos mil doce había enfermos en argixao en la fundación matia

eran once por lo tanto yo no le hubiera dicho al señor bengoa que por once tenía los enfermos dispersos no se lo hubiera dicho

la prueba de respeto que a mí me merece los pacientes de la zona de debabarrena

es que yo me he reunido con muy pocos alcaldes hasta la fecha y como usted seguro conoce el cuatro de febrero me reuní con el alcalde de eibar el señor miguel de los toyos y quiero transmitirle personalmente que tal como hice también con otro representante le transmití personalmente

de las necesidades sanitarias para agudos y para crónicos de la comarca

para valorar si era necesaria o no el hospital yo no voy hacer el informe créame usted que yo no hago los informes técnicos estoy seguro que el anterior consejero

y estoy seguro de que el que hizo el informe técnico antes y el que lo estará haciendo ahora seguramente

son muy próximos si no las mismas personas y yo lo único que he transmitido es que en principio este año

y que ni estaba prevista la financiación no quedó financiado ni la tiene y por lo demás yo creo firmemente que las decisiones referentes a nuevas infraestructuras deben estar sustentadas en necesidades ciudadanas y si la hay lo haremos y si lo hay lo haremos pero deben estar sustentadas en las necesidades ciudadanas máxime

intentaré que salvo que sea una excepción hacerlo de forma habitual

le voy a dar datos sobre la atención a los servicios de urgencia de los hospitales de osakidetza

y del que usted dice que se encuentra en estado grave y preocupante tampoco voy a incidir en lo que usted ha llamado incesantes recortes

y el treinta y uno de diciembre del dos mil doce se atendieron en urgencias de los hospitales de osakidetza ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve personas de estas ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y uno

cuatrocientos treinta y seis mil setecientos once personas se atendieron en bizkaia

se atendieron en gipuzkoa del conjunto de todas las personas atendidas en los servicios de urgencias

fueron ingresadas en alguno de los centros hospitalarios concretamente

por ciento o sea un poquito menos de quince de cada cien y nos parece un indicador objetivo del nivel de gravedad de las personas que acudieron a urgencias en araba de los ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y uno pacientes

eran niños o niñas y el resto adultos durante el fin de semana se atendieron el treinta por ciento de las mismas esto quiere decir que dos de los siete días de la semana atienden casi una tercera parte de los pacientes en cuanto a bizkaia de las cuatrocientos treinta y seis mil setecientos once

eran niños o niñas y el resto adultos

el veintinueve por ciento de las visitas y el gipuzkoa de las doscientos setenta y dos mil novecientos cuarenta y siete personas atendidas

eran niños o niñas y el resto adultos y en gipuzkoa se atendía el fin de semana el treinta y uno coma cinco por ciento más o menos algo similar

el fin de semana el testimonio directo al que usted hace referencia en su pregunta y que como afirma apareció en un medio de comunicación

la persona en cuestión acudió al servicio de urgencias y dice que permaneció doce horas lo que de antemano

porque desde luego comparto con usted para nada es el mejor ejemplo de lo que la atención en urgencias debe ser ahí estoy completamente de acuerdo con usted no estoy de acuerdo en que a partir de ese caso concreto usted concluye

completamente de acuerdo que no es el servicio que merece la sociedad vasco lo comparto plenamente ahora le aseguro señoría que este que es un caso

no es el servicio que se ofrece a la sociedad vasca ni lo es ahora

estoy seguro que la mayoría de los miembros de esta cámara han sido alguna vez ellos o sus familiares usuarios de estos servicios por lo tanto no voy a tener necesidad de convencerles estoy seguro que lo pueden comprobar pero no voy a hablar por hablar porque no me parecería serio pero le voy a dar datos concretos de los tiempos medios de espera del año dos mil doce

y me gustaría pedirle que le diera el mismo grado de confianza que le ha ofrecido a la queja concreta motivo de esta interpelación

fue de veintitrés minutos para la atención pediátrica y treinta y ocho minutos para los adultos

los tiempos son muy similares no sobrepasándose en ningún caso el tiempo medio los treinta y ocho minutos de espera tampoco en la media del conjunto de los pacientes atendidos en el hospital de basurto de bilbao en el que ocurrió el caso que hoy nos ocupa por otro lado

deberíamos tener presente que en todos los hospitales de osakidetza

se utilizan protocolos de triaje que garantizan que la demora de atención está en función de la gravedad y no del orden en que se ha accedido al hospital

que usted me pida también estoy seguro de que hay casos concretos y días concretos en que las cosas no funcionan respondiendo a los tiempos medios por circunstancias que a veces no son previsibles de hecho hablamos como su propio nombre indica de urgencias pero le aseguro

y no me parece aceptable una afirmación genérica de que los servicios de urgencia de nuestro sistema de salud funcionan mal porque bajo mi criterio

y que carecen de los recursos necesarios para ofrecer una atención adecuada permítame decirle

ante una afirmación genérica cuántos profesionales quién

está usted segura bien entendiendo que el debate parlamentario y el mecanismo de control al gobierno

sobre el desarrollo de la actividad de cada departamento no me parece serio que por un caso aislado narrado en un medio de comunicación

el hecho de que a lo largo del año se acerquen a los servicios de urgencias de los hospitales de osakidetza

creo que habla por sí solo de la valoración que los vascos y las vascas tienen de este servicio y de su sistema público de salud

que facilitemos un análisis más profundo de las urgencias

en las urgencias proporcionalmente es muy superior al de otras áreas

de la mayor parte de nuestros centros hayan sido remodeladas las de la mayoría en más de una vez

quizás conviene además de hacer un análisis exhaustivo de las urgencias y se lo digo porque lo pienso

de por qué en nuestro modelo de atención sanitaria

porque si usted va a un hospital en iparralde muy cerquita hay muchos menos recursos

y no supone un problema y aquí las urgencias a veces lo suponen pero no creo que es tanto por el tamaño de las urgencias que tenemos que tenemos en los grandes centros en donostia el hua en cruces en basurto

a la urgencia y con grandes volúmenes de cama y con grandes volúmenes de personal no creo que sea por los recursos que dedicamos a la urgencia

nosotros somos de los pocos sistemas sanitarios que para acudir a una urgencia del hospital la decisión está estrictamente y únicamente en manos del ciudadano o ciudadana y no pretendo cambiarlo pero eso es un servicio

sin pasar por otro recurso previamente aparece en la puerta de urgencias para un caso banal

por otro lado creame que la dotación en personas y en dotación tecnológica y en infraestructuras

no creo que hay fundamentalmente esté el problema

todo el mundo dice que tiene mucha más carga de trabajo de la que realmente tiene y creo que lo siente

pero creo que estamos haciendo de eso un tótem porque luego los resultados en términos de calidad del servicio que creo que la tiene no se deben a este consejero

yo soy médico de urgencias del hospital de cruces y sin embargo normalmente cuando alguien esta completamente desmotivado

un discurso de que el tótem es hacer la administración pública

yo estoy absolutamente a favor del empleo del empleo con mayúsculas

y también empleo público pero creo que yo me tengo que ceñir a

es prestar servicios sanitarios públicos y de calidad para dar empleo que nosotros somos un gran empleador pero no es nuestro objetivo principal que es que parece que a veces

y para eso en nuestra labor utilizamos muchas personas creame porque lo pienso y además estoy muy preocupado de lo que veo últimamente

no la va a ver nosotros hemos bajado el presupuesto

en el uno coma cinco por ciento y esa parte corresponde muy poco a personal entonces estamos haciendo

pero estamos magnificando el problema de una forma importante

este consejero y este gobierno van a hacer una apuesta por los servicios públicos muy muy importante y la prueba es
es un presupuesto social y es un presupuesto para que los servicios públicos no pierdan empleo eskerrik asko eskerrik asko

ubera andrea antes de iniciar tengo que trasmitirle la sorpresa por la pregunta debo trasmitir la sorpresa porque tengo la sensación de que al parlamento a explicarle a ustedes la no cobertura durante menos de noventa días por falta de profesionales disponibles de uno los treinta mil trabajadores de osakidetza

de sus funciones está de baja pero lo explicaré en enero cuando la ginecóloga titular de zornotza dejó de prestar asistencia debido a una incapacidad temporal se intentó cubrir su puesto con otro ginecólogo ginecóloga

que pudiera ser contratado si no creame que estaría contratado en un primer momento se tomo la decisión de mantener la atención en zornotza

la matrona que existía y además se garantizó la asistencia de las mujeres que requerían

por parte del ginecólogo del ambulatorio de durango landako como creo que todos ustedes conocen también como yo

entre zornotza y durando landako para un tema temporal

se reforzó el mismo con dos días de consultas de semana dos días adicionales se consideró esta solución no por este consejero sino por el jefe de servicio de ginecología y el director médico del hospital de galdakano usansolo

ya que entendían que la dotación de durango garantizaba la calidad y la accesibilidad adecuada quiero también

zornotza dispone de matrona los cinco días de la semana

y que tiene una actividad que atiende ella la matrona veintiséis consultas de media al día

es puntual y que no se deriva de una reducción de la oferta de la consulta de ginecología en zornotza sino de una incapacidad temporal por baja de la profesional

sabemos después de entrevistarme con el alcalde de zornotza que se interesó y ser consciente de que había asociaciones

desde este lunes los dos días que se habían puesto para ginecología en durango están puestos en el propio zornotza y en cuanto a la ginecóloga titular pueda volver a ejercer sus funciones volverá al mismo puesto

yo no conozco ningún servicio sanitario que tenga más profesionales sanitarios que los que necesita por ver si alguno de los que tienen fallan

no es la forma de proceder y desde luego no es el tiempo de hacerlo así por otro lado créame planificamos todo lo que podemos pero yo no soy capaz de planificar las bajas por it

no no tengo ese don ya le he transmitido

y alguno de los colectivos afectados han sido suficientes para transmitir este problema y darle una solución

dagokionez estudio bat egin genuen estudio de las condiciones de la agitación de la zona

gracias señora presidenta buenos días a todos buenos días señora consejera bien como ya hemos dicho aquí con ocasión de algunas otras aunque parece que el interés del gobierno por la aprobación del presupuesto no es mucho sin embargo sí que interesó más la puesta en escena del mismo y fue el propio lehendakari el señor urkullu el que

puso de manifiesto que además de sufrir un recorte del doce por ciento algunos departamentos como el suyo bastante más afectados que en esa cifra dijo que no se iban a afrontar nuevas inversiones y que otras iban a ser reprogramadas y reorientadas y entre estas estaba la línea tres del metro

objeto de críticas de retrasos de problemas y de cambios casi desde el principio fue objeto de crítica por parte de los vecinos y por parte de este grupo que tenía que apostaba por otra línea distinta que uniese los barrios

pero finalmente el gobierno vasco desechó llevar este metro a rekalde y cuando presentó a finales del año dos mil ocho dos mil nueve

que se iba iba a estar en funcionamiento en el año dos mil doce después lo cifró en el dos mil trece que va a ser que no posteriormente se ponía se databa su finalización en el dos mil catorce y el último cálculo es el de dos mil quince además a este retraso de la ejecución hay que unir el incremento de presupuesto el cambio de gestor los cambios que se han producido en su diseño

el trazado esta línea como otros temas han sido protagonistas de esa pelea de patio de colegio que protagonizaron socialistas y nacionalistas en el consorcio de transportes de bizkaia esta línea va a dar servicio a barrios

que vienen sufriendo trastornos incomodidades grietas desperfectos en sus viviendas únicamente soportadas en

un nuevo retraso y no sabemos si se va a producir ese retraso porque ustedes que son maestros en la ambigüedad también en el lenguaje hablan de reordenar y reprogramar así lo dijo el señor urkullu luego el señor bilbao dijo que no le constaba a la diputación que se iba a producir este retraso pero que se iba a obligar a tomar decisiones muy importantes

que se iban a llevar a cabo cambios técnicos y usted también en la presentación de los presupuestos habló de repensar las obras y replantearlas y la pregunta que queremos hacerle señora oregi señora consejera más allá de esconderse

qué significa reordenar y replantear cuáles son esos cambios técnicos y cuáles son esas decisiones tan importantes muchas gracias eskerrik asko

bai egun on berriro señora llanos muchas gracias por su pregunta

un gran interés en aprobar el presupuesto por eso nos hemos esforzado en realizarlo por eso nos hemos esforzado en explicarlo

y por eso nos esforzaremos también en sacarlo adelante

al proyecto de línea tres en las explicaciones que se han ido dando efectivamente hemos hablado de reprogramar y de reordenar o de reorganizar las obras precisamente por muchas de las cuestiones que usted ha comentado

que no estaban claras técnicas me refiero que no estaban que se habían trasmitido pero no habían sido formalmente tomadas determinadas decisiones

unos problemas de diferencias al alza de los precios

y además de todo eso tenemos una reducción como usted bien sabe en los ingresos del presupuesto que nos llevan a ser muy prudentes en las programaciones de obra

es tomar como referencia las obras que hemos hecho el monto total de obras

y para este año dos mil trece en los presupuestos tenemos un importe de veintitrés millónes de euros para la línea tres de los cuales en virtud de un convenio que hemos firmado con diputación foral de bizkaia asume el cincuenta por ciento de ese costo pero

será si todo va como tenemos planificado

a la que se ejecutó en el año dos mil doce eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea llanos andrea zurea da hitza

gracias de nuevo y muy brevemente porque me queda muy poco tiempo mire esfuerzo ni en las formas ni en el fondo porque yo creo que las inversiones son importantes

que este departamento es el último en la infraestructura y en la organización del gobierno vasco y mire por sus obras les conocerán ya le he dicho

veintitrés millónes qué quiere decir la reordenación y el replanteamiento no me ha contestado no me ha dicho si eso va a suponer nuevos retrasos probablemente sí y probablemente lo verán los ciudadanos lo que pasa que usted hoy aquí

lo que yo no entiendo es si no va a sufrir ninguna modificación esta infraestructura

y esa reorganización y por qué lo ligó a la reducción

he comentado en mi primera intervención había cuestiones que no estaban contempladas

ha habido algunos cuando hablamos de replantear y de reconducir o de reordenar las obras insisto no solamente es una cuestión económico presupuestaria que también porque estaba pendiente de

había que reorganizar y reordenar y ver hasta dónde éramos capaces de

y por otra parte había cuestiones técnicas como le he dicho usted también lo ha comentado quién iba a explotar la línea cómo se iban a abordar una serie de problemas que habían surgido

en fin hay una serie de cuestiones que había que tomar en cuenta que nos obligaban a reorganizar reprogramar los ritmos las maneras qué empezamos antes qué empezamos después quién paga cuánto paga y

cincuenta por ciento diputación de bizkaia y en el planing de obra eskerrik asko oregi andrea

el parlamento vasco desea manifestar su preocupación por las graves consecuencias tanto personales como materiales del incendio producido en el día de ayer donde cinco edificios se han derrumbado y otros seis han resultado afectados por el fuego un total de treinta y cinco familias han perdido sus hogares

situación que se puede prolongar en el tiempo por todo ello el parlamento vasco transmite su apoyo y solidaridad

y muy especialmente a las personas directamente afectadas por el siniestro así como a los tres bomberos al ertzaina y al policía municipal

en este sentido el parlamento vasco desea agradecer y ensalzar la labor de los diferentes cuerpos de seguridad que con su esfuerzo han evitado males mayores igualmente insta en las instituciones a seguir trabajando de forma coordinada